la infancia y la adolescencia son el presente ciudadanas que por la etapa vital en la que se encuentran requieren de políticas y medidas especiales para su protección y para poder ejercer plenamente sus derechos la legislatura pasada se debatió concienzudamente aquí sobre los derechos de los niños y las niñas

que proponía incorporar el principio de interés superior del niño y de la niña en todas las políticas sociales y actuaciones de la administración pública gaur eh bilduk

según establecen las normas en todas las políticas públicas y actuaciones de la administración pública incorporar el principio

y medidas en el proyecto de ley sobre violencias machistas de manera que se aplique tanto cuando se ejerce hacia las niñas y las adolescentes como cuando se ejerce violencia machista por parte de parejas o exparejas adultas hacia mujeres adultas y sus hijas e hijos menores de edad gaur

es una cuestión de derechos humanos la convención de los derechos del niño por un lado la resolución del parlamento europeo relativa a la carta europea

establecen en sus primeros artículos los principios fundamentales que deben orientar todas las acciones institucionales entre las que destaca este interés superior arartekoaren

eraginkortasunez baliatzen direla bermatu behar dela se trata de un derecho sustantivo un principio jurídico imperativo y una norma de procedimiento ello implica

que afecte a una niña o a un niño el proceso de toma de decisiones tiene que tener las posibles repercusiones positivas o negativas

que se adopte y aterrizado en el marco de las relaciones familiares y los procesos de separación y ruptura no se puede descuidar este principio y su importancia

ya sean como hijos o hijas de víctimas de violencia de género o como víctimas de violencia ejercida

pero con eso no basta y hay que seguir avanzando en modificaciones como la propuesta hoy por eh bildu y hay que seguir ahondando en la formación de todo el personal de la administración de justicia

izquierda unida propusimos y se acordaron varias partidas presupuestarias en la legislatura pasada

en el marco de la tramitación parlamentaria tendremos oportunidad además de debatir y profundizar sobre las propuestas de modificación del planteamiento que hacen y adecuar además la legislación actual

quiero comenzar mi intervención en un día como hoy mostrando mi repulsa y condena a todo tipo de violencia ejercida contra la mujer y digo todo tipo no solo la ejercida por un hombre sino también la ejercida por otras mujeres dicho esto la proposición de ley que pone sobre la mesa el grupo eh bildu bajo nuestro punto de vista es inconstitucional y lo es porque menoscaba el principio fundamental que todo estado de derecho debe preservar por supuesto me refiero a la presunción de inocencia la propuesta que han presentado

que es profundamente injusta con la mitad de los españoles y por lo tanto con la mitad de los vascos ustedes en su propuesta no tienen en cuenta la diversidad de los casos no todos los hechos tienen la misma gravedad y por ende no todos acaban en una condena lo que ustedes piden es castigar al hombre al progenitor

se erigen ustedes en jueces no necesitan que un juez dictamine si es o no culpable para ustedes

todos los derechos de ver y disfrutar de sus hijos si la denuncia resulta ser falsa castigamos al padre injustamente pero no pasa nada en su proposición de ley añaden que normalmente los maltratadores son los padres

también hay madres maltratadoras y asesinas además

no se les da tanta difusión mediática quizás por un interés oculto últimamente hemos visto casos en prensa y televisión les enumero algunos por si los han olvidado

mata en logroño a su hija de cinco años y a la abuela y luego se suicida seis de julio del dos mil veinte mata a su hijo de seis años en el centro de madrid haciéndole ingerir nada menos que ochenta pastillas catorce de octubre del dos mil veinte

mata a su bebé y se deshace de él metiéndolo en una bolsa de basura podría seguir enumerando muchos más mi pregunta es no merecen estos niños maltratados o asesinados por su madre igual protección

no merecen la misma protección sea el maltratador o asesino

esto nos lleva a reafirmarnos en que no podemos hablar de violencia de género sino de violencia intrafamiliar

suscribe un acuerdo para incluir a los hombres como víctimas de violencia de género tras el asesinato de un hombre en esta proposición

no habla solo de las niñas que sufren violencia de género también incluye a los niños claro evidentemente los niños también sufren el maltrato familiar ojalá se hiciese con los menores el esfuerzo tan grande como el que se ha hecho con la violencia de género y voy a terminar mi intervención reproduciendo unas palabras de mi amiga y compañera macarena olona como mujer

como vasca como española como política

tenemos que decir que lamentamos que sea la misma que se presentó la legislatura pasada y digo lo de lamentar porque esta iniciativa ya tuvo una tramitación

y muchos expertos sugirieron

a la mejora del texto original de la iniciativa de eh bildu la legislatura pasada que hemos visto que no se han incorporado esta vez y sí nos hubiera gustado bueno pues en la medida de lo posible sí que es cierto que ahora va a haber una tramitación que va a posibilitar esos cambios pues el grupo proponente eco de algunas sugerencias y propuestas concretas que hicieron los expertos como decía

con nuestra abstención a la tramitación de esta iniciativa de esta proposición de ley porque

la finalidad de combatir la violencia de género la lacra de la violencia de género con todos los instrumentos de todas las formas que podamos tener

una más desde luego nuestro objetivo también que creemos que es una de las finalidades también que puede acompañar el espíritu de esta iniciativa original es la de proteger a los niños a las personas que estén a cargo en una situación de violencia de género

otra cuestión distinta es la forma elegida para alcanzar dicho objetivo creemos que también como se suscitó en el debate y en la toma en consideración la legislatura pasada y

del año dos mil dieciocho la fórmula más adecuada era en ese momento estaba tramitándose la modificación del proyecto

y todos desde luego muchos coincidimos en que esa era la vía adecuada sí que es cierto que

esta tramitación decayó al finalizar la legislatura como decía no compartimos la redacción concreta

a los artículos que se pretende enmendar y tampoco compartimos que la propuesta se base en señalar por ejemplo la ausencia de una perspectiva de género de la administración de justicia por parte de los tribunales tal y como se recoge en la exposición de motivos también me gustaría por otra parte realizar varias consideraciones tal y como señala el gobierno

y también me parece importante tener la consideración como se señala también en el criterio favorable del gobierno pero que es bastante crítico como también lo fue en el año dos mil dieciocho en relación al procedimiento con advertencias sobre cuestiones concretas a las que ahora también me voy a referir

señalar que ni todos los procedimientos penales abiertos por violencia de género tienen la misma gravedad ni todas las personas incursas lo son en la misma medida

que se hace en este criterio favorable del gobierno también quisiera recordar porque tuve oportunidad

un importante esfuerzo en ese momento pues todos los que participamos en la tramitación de dicha ley

en ser muy cuidadosos con muchísimas cuestiones y en dar también un ámbito bastante amplio

a la hora de poder luego aplicar dicha ley sobre todo dar herramientas también a los

señalar que la norma general no es aplicable cuando existe sentencia firme por violencia de género ni la custodia ni las visitas ni las comunicaciones y también se dio un paso más regulando que los jueces pudieran no dar la custodia compartida si existieran indicios

y quería finalizar también haciendo referencia a que desde luego creemos que podía el grupo proponente haber mejorado dicho texto porque estamos ante un texto que ya se

propuestas que se pusieron por parte de los expertos y acabo señora presidenta también parecía importante como se señala en el criterio favorable del gobierno que con anterioridad

a la comisión de derecho civil vasco y yo creo que ahí puede haber colisión en algunos aspectos y sería oportuno si queremos sacar un texto riguroso

la propuesta original del proponente

lehendakari sailburuok legebiltzarkideok egun on guztioi bien señorías el grupo socialista acaba de emitir su voto favorable a la toma en consideración de la proposición de ley formulada por el grupo parlamentario eh bildu

la ley siete barra dos mil quince de treinta de junio y no es la primera vez que lo hace también lo hizo como recordarán muchos de los hoy presentes en esta cámara no hace tanto tiempo concretamente en la sesión de siete de febrero del

la que se debatió una proposición idéntica idéntica

un abrazo a mi compañera alexia castelo que fue quien defendió la posición de los

facilitara el trabajo fundamentalmente porque esa posición a día de hoy

y también recordarán que la llamada coloquialmente ley de custodia compartida

nunca gozó del aval de los socialistas vascos cuando fue aprobada aquel treinta de junio del año dos mil quince una ley que a nuestro juicio a juicio de nuestro grupo parlamentario entre otras cosas considerábamos y consideramos incongruente porque como ya dijimos en su momento

como por ejemplo la liquidación de las o la vivienda familiar

que a la propia guarda de los niños y también innecesaria porque ni ha superado las previsiones del código civil ni tampoco

pero la ley además partía de una promesa errónea que fue la de la presunta

olvidándose del núcleo nuclear del objeto nuclear de la cuestión que es y sigue siendo efectivamente

y desde esa premisa únicamente será la igualdad en el ejercicio de las corresponsabilidades compartidas de los progenitores desde el nacimiento de los niños

en el momento cuando se rompe la relación o cuando hayan que establecerse las relaciones paternofiliales que correspondan si el sistema de custodia

o no y no al revés que es lo que pretendían los proponentes cuando presentaron la ley los socialistas consideramos y lo hemos dicho siempre que el núcleo desde el que se debe enfocar cualquier

a la situación de los hijos y las hijas durante y después de la relación de sus progenitores debe ser insisto única y exclusivamente

como ya lo dijimos antes y volveremos a repetirlo siempre la guardia y custodia ideal ideal señorías será la única que se adecúe

individual y por tanto la mejor custodia se dará creando

difícil no es cuestión de interés hoy eh bildu nos está proponiendo una modificación de la ley en los mismos términos

de la legislatura pasada y yo les agradezco muchísimo su actitud y su acción

y también nos parece desenfocada deberían yo creo que haber aprendido

pero lo cierto es que nadie absolutamente nadie puede discutir qué es el imperativo de mejorar

que deben recibir las mujeres víctimas de violencias machistas con el fin de garantizar su seguridad y protección

la urgente necesidad de abordar la situación de las y los menores víctimas directas de la violencia machista a lo que va a contribuir sin duda ya les adelanto

con seguridad el proyecto de ley orgánica de protección integral

en tramitación parlamentaria nosotros tampoco compartimos

de los artículos que se pretenden enmendar pero sí compartimos que es necesario reflexionar y analizar la aplicación de la ley en estos en determinados supuestos en concreto en los supuestos relacionados con la violencia de género porque nuestros menores efectivamente son víctimas directas de la violencia machista de conformidad con lo previsto en el convenio de estambul el análisis y el debate nos parece absolutamente

del propio pacto de estado contra la violencia de género y además esa ley de la que les hablaba esa ley orgánica de protección integral

va a suponer el cumplimiento obviamente de un desarrollo de las medidas de ese pacto

el objetivo de esta modificación es claro pero también

que no nos abstraigamos de los límites competenciales que tiene este parlamento

pues deseamos a esta proposición de ley un recorrido parlamentario satisfactorio y
fructífero eskerrik asko para lograr ese objetivo que no es otro que la protección de los derechos de nuestros menores

buenos días gracias presidenta era necesaria la presentación de esta moción para defender el sector de la hostelería

por la pandemia y por el desinterés de este gobierno

porque no es justo que las decisiones políticas decidan quién se arruina y quién no segundo porque han sido injustamente vilipendiados

sobre la facturación de este sector eso por supuesto sin denuncia o investigación alguna

nunca son justas ni dejarse llevar por rumores o lugares comunes tampoco es una buena manera de actuar pero semejante insidia en boca de un responsable político es absolutamente inaceptable para acabar de arreglarlo hace unos días el señor ortuzar

y que no era para tanto que el pnv sabe mucho del cierre de la hostelería

y sin cobrar alquiler hombre dos cosas le voy a preguntar

primera ustedes tienen licencia de actividad en todos los batzokis es que quizás el señor urkullu hablaba de irregularidades para el sector hostelero porque los primeros que no cumplen con la normativa

son ustedes mismos más de cuarenta años de competencia desleal y ahora

para llorón vergonzante o más bien desvergonzado el pnv segunda cuántas veces durante cuántos años les ha pedido el tribunal de cuentas de españa

yo no conozco a ningún hostelero que lleve tanto tiempo investigado por la apertura de su local o por cómo lo adquirió o por cómo lo gestiona nadie aguantaría pero eso sí

y no voy a hablar más del pnv porque a mí quienes realmente me interesan

dependientes del sector de la hostelería que en euskadi están en estos momentos en dificultades económicas y que no saben cómo hacer frente al día a día de sus facturas si sesenta y cinco mil personas siguieran teniendo ingresos

no les van a dejar caer volverían a consumir en el comercio los centros de estética

estar abierta si se hubiese llegado a otro tipo de negociaciones de eso se trata señores

solo dos minutos en las calles de cualquier municipio vasco para ver situaciones de dificultad carteles de se alquila o se vende o un momento para

cuando ustedes están hablando en madrid algunos con sánchez en tono de república independiente vasca aquí los vascos están pasando penurias

no lo ponen ustedes nada fácil tantas meteduras de pata de este gobierno o de aquel gobierno los hosteleros han pagado sus impuestos se han adaptado

lo necesario para cumplir que las medidas sanitarias a las que eran requeridos para poder desarrollar su actividad

más sillas para ampliar sus terrazas cuando no podían atender dentro porque han comprado las estructuras necesarias para cerrar las terrazas las que se podían cerrar y todo eso es dinerito de su bolsillo pidieron prestamos ico pero ya no pueden ni pagarlos tan solo tienen que pisar la calle

antes palpen los ánimos de la sociedad déjense de juegos de trileros incluyan a todos y cuando digo a todos es todo el sector de la hostelería

en este pleno desde el partido popular ciudadanos les tendemos la mano para que afronten con decisión el rescate de un sector el sector de la hostelería porque rescatar a la hostelería es impedir que caigan los ingresos de miles de familias e impedir que la cadena de proveedores también caiga con ellos

están las administraciones se preguntan muchísimos vascos para qué existe lo público si no sirve para ayudar a quienes están en dificultades hoy ahora quienes están en dificultades son los comerciantes los autónomos y en particular los hosteleros

ustedes han presentado una enmienda a la totalidad los señores del pnv que más o menos viene a decir que tienen que seguir en la misma línea ver cuáles son los resultados de las líneas de ayuda que ustedes han planteado pero es que

del resultado no han ido a la calle no han escuchado que no son necesarias no han escuchado el clamor de los hosteleros

el dinero de los vascos no está para que se gaste en uno coma siete millónes para vehículos de los altos cargos del gobierno sino para que se revierta en servicios a la sociedad que es la que paga los impuestos

no se puede estar en política para vivir del cuento y hacer como que se hace

reales soluciones no más problemas o ya que estamos más excusas pregunten a las discotecas excluidas de las ayudas a la hostelería que si las salas de baile no estuvieran cerradas una vez más

a uno por aquí a otro por allá quiero recordarles que estos recintos hosteleros

las discotecas tienen que estar incluidas en el fondo de rescate no entiendo a qué se debe este juego de trileros lo repito por esto y por todas las razones expuestas

desde la oposición hemos tenido que plantear soluciones para este sector como las plantearemos y las hemos planteado para otros queremos que el gobierno vasco

del sector de la hostelería en la comunidad autónoma vasca

por los diferentes gobiernos en relación a la pandemia por covid

dicho plan debe incluir primero imprescindible la financiación por importe de doscientos millónes de euros con carácter de urgencia

a fondo perdido no reembolsable para el sector de la hostelería la mejora de las condiciones y de las líneas de financiación o moratorias de prestamos e hipotecas en unos casos depende de ustedes en otros pueden mediar apoyar o abalar en tercer lugar interlocución fluida con las diputaciones forales de los tres territorios históricos

pero también para el cambio de la normativa fiscal si fuera preciso de modo que permita a los ayuntamientos establecer

en impuestos de gestión municipal estamos hablando de ibi de iae de tasas a las terrazas de basuras

será necesario que el gobierno vasco mantenga una interlocución directa con la patronal del sector de las tres provincias en un tono diferente al del pasado solo así se podrá valorar la adopción de otras medidas alternativas de contención del covid y recibir las aportaciones

hablen con los hosteleros sean flexible permitan que los que

de comidas puedan repartir las comidas a todas horas por ejemplo qué hacen un sanitario que llega a las once de la noche a su casa podría llamar a un restaurante a un bar

pero ustedes lo impiden siguen existiendo turnos de trabajo en otros sectores por qué no en el delivery no implicaría que la gente saliera a la calle sino que se lo trajeran a casa otro de los ejes importantes que queremos es que se active la negociación con el gobierno de españa para un doble objetivo

y lograr una bonificación del cien por ciento en las cuotas a la seguridad social

un setenta y cinco por ciento de la actividad en el sector esto es lo que deberían estar negociando en los presupuestos y no otras cosas señorías del pnv

de bildu de vox apoyen a todas esas personas que lo están pasando mal hoy hosteleros mañana lo que venga

para qué sirven las administraciones en estos momentos de descrédito estamos aquí para servir para ayudar

señores del pnv son lo más importante piensen en el interés de todos los vascos muchas gracias eskerrik asko larrea

mantentzea da nosotros estamos de acuerdo con que hay que ayudar a los sectores afectados pero pensamos también que no se puede hacer esto

de cualquier manera primero porque no todos los negocios parten de la misma situación ni tienen las mismas características nosotros por eso hemos presentado una enmienda donde hemos planteado o hemos

en dos bloques digamos unas directas para el impacto que están sufriendo en este momento sobre todo efectivamente

porque están obligados a cerrar pero luego otra serie de medidas para un montón de pequeños negocios que no están obligados a cerrar pero que están sufriendo también pues el impacto de las medidas que se están tomando y que como saben

medidas necesarias para cortar la transmisión del virus pero que siempre hemos dicho que estas medidas tienen que ir acompañadas de medidas económicas porque si no pues efectivamente van a hundir económicamente

de estos sectores de estos pequeños negocios y negocios medianos planteamos

pero teniendo en cuenta también como decía algunas consideraciones en concreto pensamos que hay que tener en cuenta el número de trabajadores como de alguna manera ya se viene haciendo con algunas de las medidas que en nuestra opinión también nos han oído decirlo son escasas pero que se han puesto en marcha

nos parece importante tener en cuenta el número de trabajadores que tiene cada negocio y sobre las otras medidas las de aquellos de pequeños negocios que no están obligados a cerrar pero que se están viendo muy duramente afectados y podemos hablar desde

hasta las academias de baile hasta las agencias de viaje que han salido últimamente también a reivindicar que se están viendo muy duramente afectadas y en todos los sectores hay grandes empresas y hay pequeñas empresas

hay que tener en consideración esas características a la hora del apoyo porque no es lo mismo una empresa que cuando ha llegado esta situación tenía una buena situación económica que aquellas que puedan haber llegado

determinados beneficios anteriormente y aquellas que no pensamos que todo esto hay que tenerlo consideración y por eso hemos planteado como decía

a cerrar la facturación obviamente es cero durante el tiempo que están obligados a cerrar y además planteamos de cara a las ayudas a quienes están obligados a cerrar tener en cuenta también el proceso

ocasión cuando acabó el periodo de cierre obligado pues la desescalada también tiene unas características en las que su facturación

planteamos esto planteamos también que es necesario abordar desde los gobiernos el tema de la limitación de los alquileres

que tienen también en estos momentos y trabajar con las entidades municipales porque no solo las ayudas económicas son medidas que se pueden tomar es verdad que algunas

que si de este parlamento salía una proposición no de ley se incluyera esta cuestión nosotros vamos a defender nuestra enmienda porque no hemos negociado con nadie el grupo proponente pues ha considerado

yo creo que sí es verdad que podíamos tener diferencias concretas cuando si bajábamos al detalle pero bueno esto no ha sido así y por lo tanto nosotros vamos a defender nuestra enmienda en cualquier caso yo creo y creo que a lo largo del debate y no es la primera vez que estamos discutiendo en estos meses sobre esta cuestión creo que sí que

desde luego todavía un mayor esfuerzo para ayudar a que las medidas sanitarias para cortar el virus

de determinados sectores nosotros por eso décimos medidas para cortar el virus sí

hay que acompañarle con medidas económicas para cortar la trascendencia del virus en la vida y en el subsistir de las personas besterik ez eskerrik asko

baina konpentsaziorik gabe el catorce de marzo cierre total de los bares el cuatro de mayo abren restaurantes y bares solo para llevar

el veinticinco de mayo aforo al cincuenta por ciento dentro y fuera el ocho de junio aforo completo un pequeño período de normalidad el diecisiete octubre nuevamente un aforo al cincuenta por ciento y cierre a las doce

veintiseis de octubre toque de queda a las once siete de noviembre cierre total y a partir de que se recupere

la reapertura de los establecimientos probablemente con otro tipo de restricciones así no se puede funcionar no se puede sobrevivir no se puede mantener un negocio

las decisiones sean conscientes de ello así no se puede sobrevivir

tampoco es suficiente y estas personas no han hecho nada malo

si cayera un meteorito en una parte de este país iríamos a ayudar a la gente a la que le ha caído el meteorito encima y no serían más ni menos que otros

no es sencilla pero sí que les digo que la factura de hacer esto puede ser elevada pero la factura de no hacerlo en términos sociales y económicos va a ser mucho más elevada por tanto

y actúen y actúen con suficiencia y con celeridad eskerrik asko eskerrik asko casanova jauna euskal sozialistak corcuera andrea

presidenta buenos días los socialistas vascos hemos presentado una enmienda conjuntamente con el grupo nacionalistas vascos en la que proponemos en este caso

creada para abordar las medidas del plan de resistencia en turismo hostelería y comercio se realicen tres acciones específicas el seguimiento conjunto de las medidas implementadas por cada una de las instituciones

la evaluación cuantitativa y cualitativa de cada una de las medidas que se han adoptado y la revisión de las que se han establecido así como el análisis de posibles nuevas medidas en segundo lugar instamos al gobierno vasco a mantener la estrecha relación con el sector de la hostelería de euskadi en el marco de cooperación lealtad y apoyo en que se viene realizando

a que en el marco de la mesa de dialogo social con los agentes sociales mantenga las medidas para paliar los efectos de la crisis económica provocada por el covid diecinueve y estudie su ampliación

con la respuesta que el consejero de turismo comercio y consumo le dio el día trece de noviembre en esta cámara y que se suman a las ya aprobadas en el pleno del pasado veintinueve de octubre

el sector de la hostelería y también del comercio y también del turismo partimos de un hecho y es que la pandemia está en su segunda ola en el mundo en europa en españa y en euskadi está obligando a tomar medidas para preservar primero la salud de las personas

coinciden en que la mejor manera de frenar esa expansión es limitando la interacción social y una de las medidas más generalizadas está siendo la del cierre de la hostelería cierre que por otra parte en euskadi no se decreta ni de manera improvisada

en base a criterios sanitarios y en función de las medidas adoptadas en base a criterios sanitarios se establecen las acciones que tratan de paliar las consecuencias de la pandemia tanto en materia económica como de empleo para que las medidas que se adopten sean más eficaces se han especificado las características del sector de la hostelería vasca

por microempresas por pequeñas empresas y por autónomos

ocho mil doscientos noventa y siete tienen entre uno y tres personas trabajadoras tres mil doscientos veinticuatro

entre cuatro y diez personas y seiscientos noventa y ocho tienen más de diez personas empleadas el pasado seis de noviembre se publicaron las medidas acordadas por el labi que entraron en vigor al día siguiente y en tres días el consejero de turismo comercio y consumo presentó en el consejo de gobierno la orden por la que se regulan y convocan

orden que se publica oficialmente el dieciocho de noviembre y esa orden del consejero de turismo comercio y consumo implanta unas ayudas directas por importe de treinta

como son los veinticinco millónes de euros para ayudas extraordinarias ocho millónes de euros en ayudas ordinarias y también los cinco coma siete millónes de euros para los bonos a consumo es decir de setenta millónes de euros cuarenta y cinco se han dirigido y se dirigen específicamente al sector de la hostelería y lo más destacable por ir al trazo grueso de la última orden del consejero

es que las ayudas se dirigen a las personas autónomas a esas microempresas y pequeñas empresas y su objetivo primordial es ayudar al mantenimiento de la actividad paliando las pérdidas económicas y contribuyendo también al sostenimiento del empleo de ahí que se solicite a los establecimientos receptores de las ayudas el mantenimiento de la actividad durante al menos cuatro meses tras la reanudación de la actividad hostelera

que se levanten las restricciones estas ayudas además de que son ayudas directas son ayudas compatibles con el resto de ayudas de otras administraciones

además en aras a que las ayudas sean realmente eficaces

para la gestión urgente de estas ayudas directas y si planteamos en nuestra enmienda como primer punto la necesidad de la mesa interdepartamental e interinstitucional que esta realice el seguimiento la evaluación cuantitativa y cualitativa y la revisión de las medidas que se han establecido además

o ayudas que se van a activar o se están implantando en los diversos niveles institucionales deben coordinarse todas ellas para aprovechar las sinergias para ser más eficientes para ser más eficaces y la mesa interdepartamental del gobierno vasco ha logrado el compromiso además de elkargi para que las líneas de financiación de menos de diez mil euros solicitadas por empresas autónomas puedan ser gestionadas con la mayor celeridad

esas microempresas y las pequeñas empresas con unas condiciones muy favorables al cero por ciento de interés con un año de carencia para que puedan sostener sus negocios en plena crisis también desde el gobierno de españa

a la prestación extraordinaria por suspensión de actividad siendo la cuantía de la prestación el cincuenta por ciento de la base mínima de cotización que corresponda por la actividad desarrollada cantidad que se puede ver incrementada de darse unos supuestos específicos el ministerio de inclusión seguridad social e inmigraciones ha planteado así mismo para las personas trabajadoras autónomas

si registran una caída de la facturación del setenta y cinco por ciento respecto al último trimestre del año pasado o del cincuenta por ciento en relación con el primer trimestre de este año dos mil veinte el gobierno de españa señora larrea aprobó hace un par de semanas también la ampliación del plazo para la solicitud de avales

la extensión en tres años de los vencimientos de los prestamos

en el pago principal de los créditos aquí en euskadi señora larrea además del gobierno vasco las diputaciones forales y los ayuntamientos vascos en el ámbito de sus respectivas competencias están adoptando medidas para paliar los efectos de ese cese de actividad en la hostelería la más reciente de antes de ayer de las tres diputaciones forales

de las medidas tributarias de apoyo a los contribuyentes más afectados por las consecuencias económicas de la pandemia y así por ejemplo se amplía el límite de la exención del pago del irpf

para las ayudas extraordinarias otorgadas por las administraciones públicas a los trabajadores y trabajadoras autónomas como consecuencia de la suspensión paralización o grave afección de su actividad a causa del covid hemeretzi y también los ayuntamientos están implantando medidas

como las que se pusieron en marcha también durante el confinamiento y desde eudel el pasado doce de noviembre se remitió una carta a todos los ayuntamientos en los que se pone en su conocimiento

para que cada ayuntamiento en función de su situación y del principio de autonomía local decida en cada momento las actuaciones que considere más oportunas

al tema de la suspensión de las reglas fiscales que permiten a los ayuntamientos endeudarse para enfrentarse a esta situación también del covid los ayuntamientos señora larrea

para lo que pueda suponer en el año dos mil veinte y presupuestariamente para lo que pueda venir en dos mil veintiuno por tanto señora larrea ante la arquitectura institucional vasca resulta necesaria resulta imprescindible la coordinación

entre todas las instituciones para superar la situación que está sufriendo la hostelería y eso es lo que pretende la mesa interdepartamental e interinstitucional

y como decíamos el pasado veintinueve de octubre también se hace necesaria la coordinación y colaboración con el gobierno de españa quien en el ámbito de sus competencias

y a través de los créditos ico y su flexibilización por el covid está incidiendo con ayudas

el ocho por ciento del producto interior bruto de españa en el segundo punto de nuestra enmienda instamos al gobierno vasco a continuar la estrecha relación que mantiene con el sector de la hostelería de euskadi en el marco de cooperación lealtad y apoyo en que se viene realizando la propia evolución de la pandemia nos ha situado y continúa situándonos

se hace imprescindible con el sector y además es un compromiso personal y político del consejero de turismo comercio y consumo y en lo que respecta al tercer punto de nuestra enmienda los socialistas hemos manifestado en muy diversas ocasiones a través incluso de nuestra secretaria general idoia mendia actual vicelehendakari segunda que

por lo tanto una inversión de españa que llegó a ciento noventa millónes de euros en un mes para que no se destruyeran puestos de trabajo y por lo tanto ese plan de resistencia también contribuyendo con los erte depende de la mesa de diálogo social por lo tanto no es una cuestión de voluntad unilateral

aquí tiene que acordarse por parte de los agentes sociales de los agentes empresariales y por parte también del gobierno llegar a un acuerdo si considerasen necesario

los socialistas no nos opondremos jamás a un acuerdo de ese nivel si se llegan a

en marcha esas medidas nunca nunca oirá a los socialistas vascos
estar en contra como en otras ocasiones el partido popular eskerrik asko corcuera andrea euzko abertzaleak grajales jauna

bai mila esker legebiltzarburu andrea señora larrea sí que se ha tomado usted en serio el tema eh tanto que ha convertido esta tribuna en la primera parte de su intervención

en un comentario de cuñado de cuñada en este caso sobre licencias de actividad y demás en fin no sé si ustedes

negocietes esa capacidad de darnos clases

y no le voy a entrar a todas esas barbaridades que ha podido decir usted

me hubiese gustado oírle hablar de otro tipo de cosas yo creo que vivimos tiempos

y me hubiese gustado oírle aportar por ejemplo explicarnos qué hace el partido popular allí donde gobierna fuera de esta comunidad por supuesto es más ayer estuve tentado de ver

pero como ya le digo que estaba hoy venía yo pacífico dije no voy a hacer nada

pero en cambio esta semana sí he ido siguiendo qué hacen ustedes en andalucía por ejemplo

y no a todo el mundo o qué hacen ustedes en galicia por ejemplo donde han anunciado ayudas a pérdidas de entre doce diecisiete

millónes pero todavía no hay gallego que las haya encontrado en el boletín oficial aquí ya les hemos hablado verdad se toma la decisión se anuncia al día siguiente y a los tres días ya están en vigor ayudas entre tres mil

sumadas a todo lo anterior y en algún caso lo anterior ampliado también ya se lo ha explicado suficientemente la señora corcuera yo no me voy a repetir galicia seiscientos y esperando

perdón andalucía seiscientos y en galicia

jo du elkarbizitzan entonces el comité técnico científico ya no supongo que ni siquiera el labi

adoptar estas medidas porque la evolución de los contagios era creciente grave y muy preocupante en aquel momento otras comunidades como ya he dicho habían actuado ya de forma similar

en el sistema sanitario y garantizar la salud pública ese ha sido el criterio central y la prioridad de este gobierno y lo sigue siendo las decisiones que adopta el labi están fundamentadas siempre en los criterios de las autoridades sanitarias

de la incidencia en los últimos catorce días del índice de reproductividad y del porcentaje de ocupación de camas uci luego no hubo otro remedio que tomar

a partir de ahí se toman las medidas económicas análisis de las consecuencias de las decisiones cercanía y escucha y diálogo con el sector no sé por qué insisten ustedes en que no hay diálogo con el sector

con aquellos que les son más proclives y se olvidan de quienes han sido los

pero en cualquier caso todas y cada una de las medidas se han tomado con el conocimiento y con la participación

se sorprenderían ustedes si supiesen en algún caso cuáles son las propuestas que se han hecho por parte del gobierno y cómo ha terminado el asunto

es momento de medidas estructurales de apoyo a la competitividad de las empresas y de apoyar el mantenimiento de las estructuras empresariales

para evitar la destrucción de empleo debemos fomentar la confianza de las personas consumidoras y la activación del consumo local el compromiso debe empezar por uno mismo por una misma debe ser individual y después social

sobre ayudas a fondo perdido sobre créditos abalados que posibiliten la pervivencia del sector sobre alquileres sobre arrendamientos

pero desde el realismo la capacidad de cada administración

tribuna honetara jaisten naizenean beti eskatzen dudala egia esatea y a la sociedad hay que decirle la verdad

ni ningún otro ninguno del entorno va a conseguir que el coste de la pandemia sea cero primero

por el coste en vidas que ya hemos tenido y segundo por el coste que la pandemia

y no hay gobierno capaz de cubrir el cien por ciento de todas las necesidades que parece que es lo que de maneras diferentes traen

han sido eficientes si se han tomado con las decisiones de contraste más apropiadas

en este caso desde el grupo parlamentario euzko abertzaleak que es el momento de arrimar el hombro tenemos que ser constructivos en nuestras propuestas y sobre todo bukatzera noa

es cuando se pone a prueba el pacto social es decir los individuos reunidos

a ver si realmente esas instituciones son útiles para responder a los desafíos en estos casos sanitarios económicos y sociales que está planteando la pandemia por ello

de buscar soluciones y para eso por ejemplo está la cuestión de los presupuestos si en algún momento es apelable la responsabilidad de las formaciones políticas
en materia de dotar de instrumentos a las administraciones públicas amaitu para que hagan frente bukatzera noa

ese sentido nosotros entendemos que a pesar de que se puedan detectar determinadas insuficiencias que es momento de arrimar el hombro y de aportar

gracias presidenta buenos días señoras señores parlamentarios desde vox hemos trabajado de manera constante y laboriosa en presentar una batería de propuestas notable

una situación sin parangón y que condenaba a la ruina del sector los hosteleros desconocían que iban a tener que cerrar los negocios de un día para otro nosotros con el poco tiempo que nos dejan hablar debido al cordón sanitario al que nos tienen sometido no podemos abundar en las medidas tanto como el resto de los grupos el espíritu auzolana tan manido por el lehendakari resulta una mera fórmula retórica

entrando en materia reconocemos como acertada la propuesta del grupo pp y ciudadanos

debemos dejar la puerta abierta hasta el verano para que puedan recuperarse y tener margen de maniobra lo que ha sucedido durante este año cambiará los hábitos de todos y costará recuperar los niveles de facturación previos al covid hemeretzi

a la normalidad de verdad y no a ese desaguisado que han llamado nueva normalidad también creemos que con independencia de los euros destinados para la resistencia

que la propuesta que hace el gobierno que además la van subiendo a medida que los hosteleros van haciendo presión en la calle obligados de una forma a mendigar al ejecutivo sin embargo nos preocupa tanto la resistencia como la reactivación aplaudimos los planes como los bonos que serán de gran ayuda pero no son suficientes cuando la gente cambia de hábitos es muy complicado retomar la senda previa

para que después de este vilipendio público donde se ha culpado al hostelero de la crisis

una confianza que debe realizarse con una campaña desde todos los frentes y donde se recuerde que nuestros bares comercios y restaurantes son seguros que ir allí no es un riesgo para la salud lo repetiremos tantas veces como haga falta

no solo es el covid diecinueve los políticos al mando no habéis estado a la altura no habéis trabajado para prevenir ni adecuar

como regla y el resultado es lo que tenemos ahora ruina ruina y más ruina saldremos de esta no me cabe duda pero no se lo deberemos a ustedes

gracias señor grajales empezaré por usted porque

que no soy de tasca ni de conversaciones de tasca si soy de estar con la gente

escuchándoles y sabiendo qué es lo que quieren que se pregunte cuáles son sus necesidades y cuál es su sentir

toda mi vida porque es mi forma de hacer lo siguiente que le voy a decir es que usted

y miren en el boletín gallego de galicia perdón se lo voy a enseñar ahora mismo amplían las ayudas publicado ayer eh treinta y cinco mil euros para mejoras

en ochenta negocios porque en galicia no han cerrado todos los establecimientos de hostelería de forma general sino los que consideraban o los que estaban en zonas

pero no solo eso en andalucía se ha abierto las ayudas a ochenta y cinco sectores de mil euros ochenta y cinco sectores no solo el sector de la hostelería estamos hablando

sectores pero es que le diré que en la región de murcia también se dan ayudas entre

aquí se ha hecho le diré también que la tan denostada comunidad de madrid de la que usted habla

han conseguido tener una tasa de incidencia del covid sin

hay que mirar de verdad todos los boletines de cualquier otra comunidad en la que nosotros estemos que también se están haciendo las cosas cada uno a su manera cada uno con los recursos que tiene no me hable tampoco la señora

me decía que desde eudel se manda una notificación a las administraciones locales para que puedan ayudar a los hosteleros según sus capacidades hombre gracias

ayuntamientos gobernados por el partido popular tumbaron aquella iniciativa de quitar los ahorros de las administraciones locales que tenía en mente el gobierno de sánchez entonces claro ahora gracias a eso aquí tenemos

les recomienda eudel señor casanova y señor hernández con respecto a sus enmiendas es cierto que nosotros también creemos que las ayudas tienen que ser acorde a cada local

nuestra moción pero es cierto que hay que dar soluciones

pero en realidad los autónomos tienen necesidades y tenemos que responder a ellas porque para eso estamos aquí y a mí los autónomos vascos en este parlamento podría ponerme a hablar

los autónomos vascos creo que se tiene que hacer un esfuerzo para devolverles

que están trabajando que han pagado sus impuestos y ahora están teniendo necesidad y hoy hablo de hostelería de todos los recintos de hostelería vuelvo a repetirme no se pueden excluir a unos aquí o a otros allá no se pueden excluir a las salas de fiestas o a las discotecas porque

hay que ayudar a los autónomos a los empresarios que han apostado todo y que ahora mismo están pasando necesidad ellos y sus trabajadores porque en realidad

personas afectadas por el cierre de la hostelería en el país vasco y quiero decir y voy a terminar que es cierto que desde el gobierno vasco se ha intentado

pero es poco y eso es lo que dijimos el día trece en la interpelación que le hice al señor hurtado y eso es lo que venimos a decir hoy y hemos propuesto

y por eso les vuelvo a tender la mano a todos para que voten a favor de esta moción que hemos presentado aquí hoy para dar soluciones que para eso estamos aquí en este parlamento para dar soluciones
y mañana a quien tenga la necesidad muchas gracias eskerrik asko larrea andrea elkarrekin podemos ezker anitza taldearen ordezkaria hernández jauna

nosotros que somos buena gente hacemos una enmienda

no ha habido ninguna oferta de negociación la iniciativa es suya yo agradezco que nos tienda la mano pero no me pida que la manera de tender la mano sea que les votemos y ya está eso es muy complicado

nosotros sí lo hemos recogido porque para nosotros eso es importante no se trata de soltar dinero público

nosotros pensamos que hay que recoger esos criterios el número de trabajadores de facturación etcétera

y por eso también planteábamos dividir las ayudas en dos líneas diferentes porque también es verdad que quienes están cerrados por obligación es facturación cero

pero luego hay un montón de pequeños negocios medianos negocios que no están obligadas a cerrar pero que se están viendo afectados por dos tipos de medidas

de los de la hostelería proveedores o todo lo que se mueve alrededor de la actividad que hay en la hostelería pero luego también por las limitaciones de movimiento entre municipios

en estas segundas además nos parece especialmente importante tener en cuenta esos criterios porque además estos sectores y en el de la hostelería concretamente tampoco el tamaño del local usted hace mención al tamaño del local el tamaño del local tampoco nos dice cómo es el negocio

o medianos locales que son propiedad de grandes grupos y no me estoy refiriendo solo a mcdonalds

creo que todo esto hay que tenerlo cuenta y para nosotros desde luego esto es importante nosotros hubiéramos negociado con cualquier grupo con el suyo y con cualquier otro de esta cámara sabemos que ahora no hay mayorías suficientes

la iniciativa del gobierno que realmente yo creo que lo que dice es hacer algo que ya están haciendo y por lo tanto creo que no es válido pero bueno nosotros agradecemos su posición pero eso no es tender la mano tender la mano hubiera sido que pudiéramos llegar a un acuerdo por eso nosotros vamos a votar nuestra iniciativa

qué pasa si mañana se decreta el cierre de la hostelería como se estaba decretando en esos momentos en cataluña

ya hemos visto lo que ha pasado se decretó el cierre de un día para otro

y de prisa y corriendo improvisando a posteriori una serie de ayudas

y falta de respuesta yo ahora les pregunto a ustedes señores de los grupos que respaldan al gobierno qué pasa si

se prolongan durante meses después de que se les permita volver a abrir sus establecimientos qué pasa si la reapertura es con restricciones que impide a esos negocios subsistir mediante su mero funcionamiento profesional qué pasa

que si no se establecen unas ayudas suficientes durante el tiempo que duren esas restricciones se van a sumar las pérdidas acumuladas en esos meses a las que se llevan acumulando durante casi un año y que por tanto otra tacada

y se lo pregunto ahora qué pasa si vamos a afrontar unos meses con restricciones a la actividad de la hostelería a las personas trabajadoras del sector de la hostelería se les ha obligado

a sufrir una auténtica montaña rusa económica y emocional antes he leído el listado de cambios en la normativa y las restricciones aplicables

las condiciones de su negocio han tenido que decidir el número de plantilla que están en condiciones de soportar

qué tipo de créditos piden ustedes saben la carga emocional

además del quebranto económico y que luego tengan que aguantar que importantes responsables políticos de este país

que tengo cien bares cerrados eso es humillar eso es humillar eso es una falta de empatía hiriente

usted señor consejero se quejaba cuando le decía que no que le reprochaba que no había hecho nada han hecho muy poco han hecho muy poco

ocho meses anteriores pero aun así sigue siendo insuficiente y se lo estamos demostrando les estamos trayendo datos el sector se los está dando a ustedes yo no niego que haya diálogo no niego que haya diálogo otros lo negarán yo no niego que haya diálogo me consta que hay relación y que hay diálogo y que hay transmisión de ideas

de nuevo cuño que han surgido al hilo de esta crisis y con las federaciones previamente establecidas y de ese diálogo sé que ustedes están en contacto pero ese no es el diálogo que necesita el sector de la hostelería badago existitzen da dagoeneko egitura formal bat

sí gracias presidenta señora larrea

vasco mire aquí nadie se está poniendo de perfil el gobierno vasco afrontó

momento en el que se produjo lo ha hecho además con ayudas están

del día veintinueve de octubre lo primero es la salud y por lo tanto también hay un plan de resistencia planteado por el departamento de turismo comercio y consumo del gobierno vasco para intentar paliar las medidas sanitarias que están provocando restricciones en la actividad económica de algunos sectores en este caso el de la hostelería

ha intentado coordinar y está intentando coordinar la mesa interinstitucional con todas las medidas de las instituciones gobierno de españa

ayuntamientos y diputaciones forales que día a día van sacando

intentar paliar las consecuencias de las medidas y restricciones

contra el covid y esas medidas van día a día le he comentado las diputaciones forales antes de ayer las medidas que estaban implantándose por eudel y creo que a alguien el que le ha chivado el tema

hablo del concierto económico que ha permitido el mayor endeudamiento para los ayuntamientos vascos

ni con la suspensión de las reglas fiscales a ver si nos vamos un poco centrando y enterando de qué van las cuestiones por lo tanto vuelvo a repetir un plan de resistencia

en los últimos días para ayudas directas del gobierno vasco que además son ayudas que pretenden ser

por lo tanto cuarenta y cinco millónes de euros de momento destinados exclusivamente al sector de la hostelería mire yo tengo aquí cuáles son las ayudas que están recibiendo determinadas comunidades autónomas usted hablaba de galicia bueno pues aquí pone medidas genéricas para sectores afectados por el covid

murcia quince millónes de euros a fondo perdido quince millónes lo demás son todo prestamos por lo tanto en fin nosotros estamos hablando de treinta millónes

alardes de qué están haciendo otras comunidades autónomas a mí me preocupa lo que ocurre aquí y creo que el gobierno vasco está dando respuesta a las necesidades que está teniendo la hostelería seguramente

somos quienes nos estamos dedicando al tema del turismo del comercio y de la hostelería

ya vaya girando porque en un principio era que el gobierno no había hecho absolutamente nada no había ninguna medida puesta no había ningún plan de resistencia bueno ahora ya se va avanzando algo vamos caminando igual dentro de unos cuantos meses no tenemos que hablar de este tema con lo cual yo me alegraría gobierno de españa le comentaba antes entre la prolongación de los erte la flexibilización de las cuotas a la seguridad social y además en el tema del ico la ampliación

en total ayudas por el ocho por ciento del producto interior bruto de españa oiga eso no es peccata minuta eso no es desinterés del gobierno de españa por un sector que está realmente sufriendo unas consecuencias importantes tema interlocución del sector y es que yo creo que en un principio había pensado que le había entendido mal pero veo que no por lo que le estaba también comentando el señor hernández

desde el primer día desde el primer día y además es más

y con el consejero de turismo comercio y consumo por lo tanto yo no sé qué está usted intentando es más de esa interlocución y de recibir el tema de la preocupación por la cuestión de los alquileres soy

y que incluso el propio consejero están trabajando en intentar encontrar una fórmula para la cuestión de los alquileres y espero que en poco tiempo pueda verse implantada o al menos aplicada y la prórroga de los erte no depende del gobierno de españa depende del acuerdo

entonces no desviemos tiros ese acuerdo no puede imponerse no puede lograrse por imposición de una de las partes

y es más primero habrá que ver si se necesita y son necesarias esa prórroga del erte mire señora larrea frente a su diagnóstico

el compromiso del consejero y el compromiso del departamento de mantener seguir manteniendo esa relación con el sector el esfuerzo de este departamento no acaba aquí

de que los escenarios son cambiantes y que por lo tanto se van aplicando nuevas medidas del veintinueve de octubre a aquí tenemos un nuevo plan de treinta millónes de euros de nuevas medidas de las diputaciones nuevas medidas de los ayuntamientos no nos haga usted creer que estamos en un momento están con una foto fija y que aquí no se mueve nadie claro que nos movemos yo no sé qué es lo que no entiende

mire menos frivolidad en las formas de su discurso y yo le pediría más responsabilidad y rigor en los planteamientos que usted realice porque no tiene ningún aval por detrás de la fórmula que usted había planteado no hay ningún informe que avale

mire señora larrea nosotros escuchamos a la sociedad y la sociedad nos escucha a nosotros por no salir simplemente en el territorio mire yo aquí tengo diez antenas

estamos en continuo contacto con esta sociedad hasta con las asociaciones de la hostelería estamos en contacto fíjese usted todavía no he conseguido

me expliquen de dónde saca usted los doscientos millónes de euros cuando ellos pedían ciento ochenta y dos y nosotros ya dijimos que no estábamos de acuerdo con cómo se había sacado esa suma no sé cómo ha llegado usted no sé si ha metido un diez porque los del pp somos así lo de groucho marx y el

no sabemos cómo ha llegado a mí este debate la verdad como ya lo tuvimos antes igual es por eso

poquitas cosas claras una que a usted le preocupan mucho que no es tasca y que le preocupan mucho las discotecas yo en eso soy de tasca probablemente el otro día el señor tellería decía

porque utilizaba mucho la sanidad y a mí probablemente me hayan hecho portavoz de hostelería

pues igual también pero entre otras cosas precisamente por esa interlocución o por ese ámbito de cercanía

en lo más cercano en la vida de poder testar captar con los amigos

por suerte para este país no está como dicen ustedes está muy mal la situación es muy complicada es muy complicada

es quizás más complicada en todo lo que está en torno a la hostelería porque la hostelería está recibiendo ayudas la hostelería tiene

están los distribuidores quizás todo ese mundo esté peor está fatal la aeronáutica porque a pesar de las ayudas de macron

está mal todo y yo insisto desgraciadamente ni este gobierno ni el de angela merkel ni el de macron ni el de sánchez ni ningún otro

pasar de rositas por la crisis pondremos parches mejores o peores

por lo visto en lugar de ayudas de entre tres mil y cuatro mil euros a la hostelería que es de lo que estábamos hablando hoy a fondo perdido debe ser mejor abrirlo a ochenta y cinco no sectores categorías y dar mil a cada uno

coño pues en andalucía con seiscientos van a montar fiestas por lo visto

de su moción a pesar de esa apelación que nos hacía porque en fin

no tendemos a fake news nos leemos las cosas

también y como le decía antes seguimos esperando a que

millónes para pérdidas y para que ellos efectivamente se materialicen

aquí hay que ayudar a todos y más y en galicia lo solucionamos todo

de los que han cerrado no tenemos noticia en cualquier caso como le digo no solo leemos los boletines de por ahí sino que leyendo

y os lo repito porque es que estoy nerviosa la verdad y no lo puedo negar y

hablar de cualquier cosa y de lo que os quiero hablar hoy es una de las cosas a las que más importancia concedo y

y siento muchísima responsabilidad una de cada dos mujeres ha sufrido violencia a lo largo de su vida

treinta mujeres asesinadas en los últimos diez años en euskadi treinta menudo chorreo de datos a mí

y yo sé que a vosotras que a la mayoría de vosotras también eh izan ere

eso es solo la punta la violencia machista es que las mujeres trabajamos siete horas más

y que los trabajos rutinarios en el hogar los hagamos solo nosotras y los lúdicos ellos

y esto quiere decir señores que existe el patriarcado vasco nada de o muy poco de bases de igualdad por cierto la violencia machista es la mitificación

de un futbolista obviando otros capítulos públicos de su vida elkarrekin podemos izquierda unidak mozio bat ekarri du gaur

que no vamos a terminar con la violencia con esta moción ni tampoco con políticas

por muy eficaces que sean no lo vamos a hacer porque el patriarcado como os decía antes es un sistema

que se sostiene entre otras en la impunidad y en la complicidad pero bueno no vamos a terminar con él pero no podemos ser ni cómplices ni alimentar esa impunidad

eta horretan bizitza doakigulako la violencia contra las mujeres siempre ha sido desgarradora pero ahora además con una pandemia

toma más fuerza y se está manifestando de otras muchas maneras es más invisible y además tendemos a olvidarnos de ella con la excusa de la emergencia sanitaria

como hacer un informe para saber qué atención se ha dado a las violencias machistas

durante las nuevas olas de covid argazki garbia behar dugu politika

duen nahiak baliabideak eta bitartekoak izan ditzan lan egitea confío de verdad en los acuerdos pero confío yo creo que eso os lo he trasladado y he confiado

por eso quiero poner en valor vuestra voluntad también

porque yo sé que ayer más de una se perdió la manifestación por estar trabajando en este texto y bueno y porque

porque a la ultraderecha le importa bastante poco y además

pero bueno espero que algún día cambien la verdad también tengo esperanza y mientras tanto nosotras a lo nuestro

y un día después del veinticinco de noviembre el acuerdo de todas nuestras fuerzas democráticas

va a mandar un claro mensaje a la ciudadanía vasca de este verdadero compromiso que tenemos con este tema y vamos a mandar

dela ayer se celebró el día internacional contra la violencia de género y

pero sin duda todos los días tienen que ser los días contra la violencia de género y yo ayer decía

es una cuestión que nos incumbe a todos y estoy absolutamente convencida

como sociedad y tengo que decir que desde este grupo hemos hecho un esfuerzo por alcanzar un acuerdo como creo que lo hemos hecho todos los grupos o casi todos los grupos con representación en esta cámara y creo que es una buena noticia

a tantas mujeres vascas que están sufriendo que siguen sufriendo está lacra que si cabe además se ha podido ver agravada por la propia crisis

hay que recordar que esta es una violencia que se sufre en la intimidad

en silencio y como recordaba la señora gonzález no se denuncia todo lo que se tenía que denunciar tres de cada diez son las denuncias que se interponen si hablamos de diez situaciones de violencia de género se interponen tres denuncias según un informe

humanos y como decía esta situación se ha podido ver agravada por la propia crisis del coronavirus

eta teknologia berriak ematen dizkiguten aukerak ere ikustea para nosotros y por eso enmendamos aunque coincidíamos con muchas de las propuestas de la iniciativa original presentada

cuestiones como son todo lo que tiene que ver con

la revisión de los protocolos de actuación desarrollar programas específicos de formación para el personal y también que se pudieran perfeccionar canales de comunicación

o son cuestiones que se recogían en la iniciativa original pero sí también nos parecía

lo que tiene que ser lo que tiene que ver con reforzar programas de apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género en el ámbito de la sensibilización prevención atención y protección y también

a las mujeres pero que esa atención aparte de ser integral también se mejore la capacidad de actuación de las administraciones públicas siendo una actuación más efectiva y más rápida nos parecía también importante otra cuestión y también agradezco que las personas que hemos negociado en los distintos grupos esta iniciativa este acuerdo bueno pues al final

el que se puedan seguir diseñando esos programas tan importantes en el ámbito educativo para seguir educando en valores como la igualdad la tolerancia el respeto

recorrido en relación a la violencia de género pero sin duda pues viendo las cifras que también se recordaban aquí y la situación de muchas

camino por recorrer y creo sinceramente y por eso vuelvo a agradecer el esfuerzo que hemos hecho

las representantes en esta cámara por alcanzar este acuerdo porque creo que pone

supone un paso más desde luego en la adopción de esas medidas o seguir adoptando mejor dicho medidas desde las instituciones para bueno poder paliar este problema que sufre la sociedad y también

a muchas mujeres que no hay que olvidar que si ya lo pasan mal en estas situaciones también esa situación se ha podido agravar por la crisis del coronavirus orduan eskerrik asko

sí gracias presidenta desde dos mil tres han sido asesinadas mil setenta y cuatro mujeres y desde dos mil trece trescientos

han quedado huérfanos en dos mil veinte han sido asesinadas cuarenta y uno mujeres y veintinueve niños y niñas han quedado huérfanos

contra la violencia de género constituyó un cambio de paradigma que hizo posible

y específico de violencia que es la que se ejerce contra las mujeres por el mero hecho de ser mujeres y que implica una violación de derechos y debemos seguir avanzando en esta línea asimismo y continuando con la senda marcada el pacto de estado es la muestra del consenso de todos los grupos parlamentarios entonces representados en el congreso de los diputados

y que continúa aspirando a este consenso por la evidente necesidad de combatir la violencia de género que continúa siendo realidad para muchas mujeres el pacto de estado sobre violencia de género

para empezar a desarrollarse nueve meses después de ser aprobado el partido popular o no había desarrollado prácticamente ninguna de las doscientos catorce medidas que se habían aprobado en septiembre de dos mil diecisiete en el congreso de los diputados desde entonces el buque ha sido evidente

interrupciones debidas a diferentes convocatorias electorales

las políticas feministas y entre ellas la lucha contra la violencia machista

de género en presencia de la perspectiva de género en las políticas que se impulsan desde el gobierno de españa y desde el gobierno vasco la emergencia sanitaria que estamos viviendo en los últimos meses ha significado para miles de mujeres

una situación de doble dificultar en primer lugar

implica un aumento de riesgo de parecer estas agresiones físicas y en segundo lugar

tanto para la víctima como para sus hijos al no existir tregua dentro del confinamiento y también una mayor dificultad para la denuncia

aumenta es por esto por lo que tanto desde el gobierno de españa como desde el gobierno vasco se han llevado a cabo múltiples campañas informativas

y disposición de nuevas herramientas de recursos para hacer más fácil ante situaciones de peligro y en confinamiento se ha constatado que durante la pandemia ha aumentado en este periodo el uso de medios telemáticos y del teléfono en detrimento de las denuncias que han disminuido por la dificultad

pey pese a que todos los servicios relacionados con la violencia de género han sido decretados como esenciales

finalizado el confinamiento y y también se ha producido luego un incremento importante de separaciones matrimoniales a lo largo de este año

y lo continuará haciendo desarrollando legislativamente el pacto de estado para adecuarlo al convenio

del poder judicial que posibilita una mayor y mejor formación de los operadores jurídicos

aprobada este mes de noviembre porque es evidente que sin educación

sin coeducación no hay prevención posible de violencia de género y este nuevo texto

de género y prevención de la violencia hacia las mujeres en todas las etapas educativas cumpliendo así las propuestas de ámbito educativo incluido dentro del pacto de estado

muchas mujeres precisarán de especial atención por parte de los gobiernos y dentro de esta nueva situación poder contar con el ingreso mínimo vital también será

mujeres es importante contar con recursos para ello además de las partidas incluidas dentro de los presupuestos generales de nuestra comunidad autónoma

vengan del pacto de estado que se sumarán a los recursos propios de cada comunidad autónoma

y acordada con ellas los socialistas vascos consideramos que ni antes

los recursos por parte de ninguna administración en el marco de competencias destinados en la lucha para la eliminación de la violencia de género porque

a aumentar las partidas destinadas precisamente para esta finalidad ningún gobierno debe recortar

lucha hoy hemos realizado un esfuerzo para alcanzar este acuerdo los diferentes prácticamente todos los grupos parlamentarios de esta cámara salvo vox y creo que es importante este consenso

consenso después del esfuerzo realizado porque como he dicho también en mi intervención en el ámbito de la lucha contra la violencia de género creo que es fundamental esos consensos y en esa enmienda transaccional recoge

de la propuesta original con algún cambio

a un estudio pero es importante señalar que dentro de este año emakunde realizó un estudio entre los meses de marzo y mayo y ahora va está procediendo y va a proceder a realizar el contraste con asociaciones

para ver la situación actual una vez finalizado todo el confinamiento y luego con esas conclusiones seguir avanzando incluyéndolo

en otra serie de cuestiones como las que se recogen dentro de la propia enmienda transaccional es por ello

y luego de la utilización de esas conclusiones para seguir avanzando y eso es mucho más real todo el trabajo realizado

y la utilización además de ese trabajo para seguir avanzando a futuro también hacía referencia dentro de la enmienda

que se aumenten esos fondos públicos bueno ese compromiso se recoge también

pero además es la línea como he indicado que se está siguiendo en los presupuestos generales de esta comunidad autónoma como no podía ser de otra manera y luego recoge también

mucho más amplia porque ha ido recogiendo las aportaciones de los diferentes grupos que la enmienda inicial con lo cual yo creo que el resultado que

parlamentarios de esta cámara pues se ha quedado plasmado ahí

y es un camino y marca el camino a seguir

y recoge también pues todo el trabajo realizado y que se está realizando también en la lucha contra la violencia de género por mi parte

este esfuerzo para conseguir este consenso también porque es el camino a seguir porque no podemos dar pasos atrás en la lucha contra la violencia

discursos que nos pueden distraer
del correcto camino nada más y muchas gracias eskerrik asko sánchez andrea

zera dio zati honetan ellas perdieron sus vidas por orden de un caudillo

él fue rafael trujillo él se enamoró de una y al no ser correspondido descargo toda su furia porque se sentía ofendido

la maté porque era mía o la maté porque no quería

yo me voy a ceñir al título de la iniciativa en este caso que es políticas para reforzar la prevención atención y protección

dicho esto la presente iniciativa es el ejemplo perfecto de cómo la ideología la de género en este caso contamina absolutamente la percepción de un problema

no cabe duda me refiero a la justificación de la moción de que en la crisis que estamos los colectivos más vulnerables son los que más sufren son los que menos posibilidades tienen de defenderse ante una crisis

en este punto ustedes incluyen a las mujeres en general como las que más sufren ante la covid diecinueve

y la mujer es la que más sufre en aras del rigor hay que decir que esto no es absolutamente así la ideología de género les ciega en el caso del covid diecinueve hay una brecha de género pero contra los hombres

y eso a pesar de que nosotras somos mayoría dentro del rango de la tercera edad pero pongamos un ejemplo sin ánimo de ofender de cómo les ciega esta ideología

como si de un todo homogéneo se tratase y esa es la esencia de nuestra posición en contra de los asuntos de la ideología de género las mujeres no son un todo homogéneo no hay una dialéctica de lucha de sexos es equiparable por ejemplo la situación de la reina sofía

irene montero corina con la de luisa la panadera de mi barrio

o con la de josune una conocida que ha sufrido malos tratos y está en una situación muy complicada la respuesta es clara no es lo mismo

yo también quiero una sociedad sin violencia se lo aseguro y lo sabe usted bien porque lo hemos comentado

sin ningún tipo de violencia ni contra la mujer ni contra el hombre ni contra los niños en este caso niñas y niños ni contra los homosexuales

es generar una sociedad en la que no haya ningún tipo de violencia porque como he repetido en ocasiones muy ya

soy la primera que condeno la violencia de género y lo digo con la boca bien grande lo condeno pero también el resto de violencias eskerrik asko eskerrik asko martínez andrea

y que han conseguido que se escuchen aquí y que se escuchen a través de estos micrófonos indarkeria sistemaren ispilu vamos a defendernos

aquí están tus hermanas nos queremos vivas nos queremos libres y

porque la poesía también es reivindicación y la poesía también es política

ella le pregunta cómo te proteges de una violación él guarda silencio un rato

evito ir a la cárcel ella le pregunta de nuevo quieres saber lo que he hecho o lo que he evitado hacer

entonces afirma con la cabeza ella dice no hablo con extraños no salgo sola por la noche

llevo puestas mis zapatillas de correr aparento que sé dónde voy

hoy traemos a esta cámara una reivindicación que llevamos haciendo ya muchas semanas una moción en aras a una mayor transparencia en la gestión de la actual pandemia esta que nos ha cambiado la vida y que nos obliga a mirar al futuro con temor e incertidumbre la iniciativa que hoy planteamos tiene como único objetivo saber saber nosotros y que la ciudadanía sepa

que afectan de forma muy notable a ciudadanos en general a autónomos empresarios profesionales de muy diversa índole personas mayores residenciadas niños adolescentes y jóvenes a todos compartir la necesidad de una determinada medida es la mejor garantía de que va a ser cumplida

entender qué se pretende con él aceptarlo como adecuado y cumplirlo esta es la mejor manera de hacer sin duda pero hay otras imponer

con amenaza de multa a la larga el resultado siempre es peor desde el inicio de la pandemia hemos escuchado a cargos públicos de todo tipo y condición referirse a informes de expertos como aval de sus decisiones pero cuando dichos expertos realmente existían comprobábamos que sus posiciones eran múltiples

muchas de ellas absolutamente contrapuestas de ahí que los mensajes que ha recibido la ciudadanía hayan sido contradictorios que hayan amplificado la incertidumbre

ha hecho la interpretación que ha querido ha confiado en un criterio que en cada momento ha considerado útil y han primado unos intereses antes que otros y siendo así muchos nos preguntamos en cuál de esas opiniones

después el gobierno vasco decisiones todas ellas de enorme repercusión en la ciudadanía en nuestro modelo económico y social en repetidas ocasiones hemos solicitado a la consejera vasca de salud la señora sagardui

el labi sabedores de que no todos eran coincidentes que las soluciones planteadas por profesionales sanitarios o expertos en gestión económica

queremos conocer los informes y queremos saber qué criterios han servido para tener en cuenta unos y descartar otros qué ha valorado el grupo de personas que conforma

solo así conseguiremos erradicar esa imagen de improvisación que en muchos momentos ha dejado la gestión de la pandemia

confío en que esta moción sea aprobada por los grupos que en repetidas ocasiones han elevado al gobierno una petición idéntica

seguro que también psoe en aquellas comunidades en las que no gobierna llevamos mucho tiempo hablando de transparencia ha llegado el momento de votar por la transparencia de apostar por la transparencia no tener acceso a dichos informes

no conocer las posiciones de cada cual y los debates que en su seno se producen se llama opacidad también lo es que el máximo responsable de las decisiones

transparencia en aras de una mayor credibilidad certidumbre para una ciudadanía que merece ser considerada y que rechaza la imposición no explicada

buenos días gracias señora presidenta consejera señorías bien señora martínez el grupo popular ciudadanos

cree que es bueno que los acuerdos de los órganos de la administración y los

y que el fundamento de sus deliberaciones de esos órganos también sean conocidos y analizados y usted además tiene derecho a ello

con una solicitud de información documentada en relación con esta cuestión quizá hubiese sido más eficaz que esta

reglamentariamente como parlamentaria usted tiene derecho a la información como parlamentaria y a hacer un correcto uso de la misma y las leyes

se lo garantizan y le protegen incluso si alguien no accede a ello le protege de una manera mayor entiendo que debe

de entiende mi grupo que debe de haber absoluta transparencia en lo que se decide en el

en el labi debe de haber absoluta transparencia y que se debe dar cuenta de las deliberaciones se debe dar cuenta de los acuerdos pero también

a esas decisiones eso está claro comparto con usted la inquietud sobre el contenido de esos informes técnicos comparto la inquietud de qué se habla

ya que señora martínez el precedente en esta cámara no es nada bueno como todos saben el consejo asesor de enfermedades infecciosas

y que tenía que haber trabajado en la primera oleada de la pandemia

no informaba no se reunía todo lo hacía un comité político está bien claro que eso fue así

constatar todos los grupos que estábamos en la diputación permanente en ese momento ahora bien parece que de alguna manera algo ha cambiado parece que

participan en las deliberaciones en las discusiones en el labi y nosotros desde luego lo que queremos en primer lugar es proteger y preservar a esos técnicos

científica de actuación de decisión de información de dictamen pero también la base el fundamento de lo que esos técnicos informan esos científicos informan y que apoyan las decisiones políticas eso está claro por eso

no sé si trasladar a la sociedad debates de esos órganos

o la contraposición de informes es lo más conveniente o si lo mejor es saber el fundamento definitivo de los acuerdos el fundamento definitivo la base

de las decisiones por eso nuestra enmienda que es coincidente con el espíritu de su iniciativa va en favor de la explicación en este parlamento de las decisiones también técnicas o de las decisiones científicas a través de los responsables técnicos y

en esta fase de comparecencias parlamentarias aprovechar las comparecencias semanales de la consejera para dar información también técnica o científica de esas personas que componen el labi cuando el labi se reúna y tome decisiones y hacerlo precisamente

que sería lo fundamental yo creo que a los ciudadanos y ciudadanas nos gusta mucho oír a los técnicos a los científicos a las sociedades científicas médicas farmacéuticas dando sus explicaciones y aportando las valoraciones que sustentan las decisiones

a los políticos y a los órganos políticos que tienen que decidir y más

oír a los técnicos a los científicos en momentos de tanta incertidumbre y tanto desconcierto como este que vivimos todos los días oímos en los medios de comunicación en la radio a técnicos a científicos oímos a epidemiólogos a virólogos a expertos

a responsables de farmacias hospitalarias o a responsables de farmacias comunitarias no y atendemos a sus explicaciones expertas en relación con muchas cuestiones en relación con los pcr los test serológicos en relación las

y los estamos oyendo porque necesitamos esa información los ciudadanos y las ciudadanas de este país y todos no los que estamos afectados

proponemos que sean los técnicos los que nos cuenten

de lo que son los acuerdos políticos y las decisiones políticas y en el marco de esas deliberaciones no sé si estrictamente en modo acta o sí en el modo explicativo en modo de cómo se toman esas decisiones pues en ese sentido las explicaciones de los técnicos y del labi también

eco también y canal de comunicación de esas decisiones técnicas o científicas que fundamentan decisiones políticas y serán muy importantes

esos informes técnicos también en el parlamento acompañando a la consejera semanalmente o cuando se reúna el labi en relación con esas cuestiones por dos factores que son dos factores esenciales el primero es un factor político democrático y

cierta y transparente por certeza por certidumbre y por transparencia saber de qué se habla saber qué se pone sobre la mesa y el segundo

muy social es el hecho de conocer también esas opiniones es un factor de tranquilidad a la sociedad

de las decisiones políticas la base técnica de esas personas que se juegan su prestigio que ponen su profesionalidad y

y sobre la decisión política o sea que en ese sentido

debe de funcionar así y por eso hemos pedido y por eso hemos trasladado una enmienda de totalidad en relación con que recogiendo las posibilidades de saber de qué se habla entendiendo también por eso decía que usted como parlamentaria también puede solicitar y además es que el gobierno no se puede negar

sobre decisiones que se toman en órganos del gobierno órganos auxiliares del gobierno o asesores del gobierno eso está claro pero sí que en el marco de la información que podemos recabar en este parlamento yo creo

en sus comparecencias semanales ante la comisión de salud a la consejera de salud

una representación del equipo técnico del labi la que se considere oportuna en función de las decisiones y de los acuerdos que se han tomado del plan de protección civil de euskadi

analizados en dichas reuniones para que dé cuenta de la base del fundamento de las decisiones políticas que se han tomado entendemos que esa es una buena salida entendemos
que es perfectamente compatible con lo que usted ha propuesto y defendemos nuestra enmienda de totalidad muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

desde el escaño si me lo permite señora presidenta nosotros no hemos presentado enmienda

iniciativa porque no queremos contribuir a la estrategia de vox de lanzar una especie de sombra de sospecha sobre las decisiones que se están tomando en relación a la pandemia decisiones en criterios científicos en la evidencia y además que se ponen de manifiesto que son acertadas en tanto en cuanto hemos conocido ayer mismo nos lo explicaba la sailburu cómo las decisiones que se han ido adoptando pues han permitido que se baje

de contagios y en los porcentajes que estamos tratando todas las semanas en la comisión de salud decisiones además que son públicas porque

y además decisiones de las que se informa semanalmente en este parlamento por cierto y esto lo quiero recordar a propuesta del partido socialista y del partido nacionalista

de todas estas decisiones y además me resulta curioso que quien se queja en esta iniciativa de falta de información

pero no ha hecho ninguna pregunta por escrito ni ninguna solicitud de información documentada pidiendo esa documentación

porque como lo acaba de explicar el señor barrio efectivamente el gobierno

y en ese momento estará accesible para cualquier ciudadano o ciudadana

jugar a este juego a esta sombra de sospecha que vox pretende desplegar y votaremos en contra de la iniciativa nada más y muchas gracias eskerrik asko rico jauna

buenos días sin duda este parlamento nos da muchas sorpresas esta resistencia de los partidos del cordón sanitario a la transparencia en la gestión de la crisis sanitaria a hacer público de nuevo insisto los informes con los que trabaja el labi y las actas de estas reuniones sorprendente que con argumentos peregrinos o con silencios defiendan la opacidad

haga y deshaga a su antojo sin explicar sin rendir cuentas ante nadie esa es la consecuencia de su postura

de publicar en irekia informes y actas no de trasladar a la sociedad interpretaciones

sorprende también que aún haya partidos que esgriman una supuesta pulcritud democrática para rechazar propuestas que ellos mismos podrían presentar propuestas de un partido vox que ha llegado aquí avalado por el voto de miles de personas con riguroso respeto además a las reglas del juego

habría hecho esta propuesta estoy segura de ella si fuera pero claro es gobierno y ahora es un firme defensor de la opacidad y de la ocultación de los criterios que les llevan a tomar decisiones que en tantas ocasiones ha pedido

en contra de sus propios intereses pero claro todo vale contra este fascismo inventado contra el que pretende salvar las vergüenzas ustedes los partidos del cordón están diciendo no a la transparencia en la gestión de una crisis que está dejando víctimas de todo tipo están diciendo sí a la opacidad e insisten en decir no a la democracia manteniendo repito un cordón sanitario

hoy sabemos que el pnv es quien lo lidera precisamente el partido más interesado en ocultar qué informes tiene

qué tipo de argumentos se manejan en el labi para la toma de decisiones si una formación que se dice seria y respetuosa

pero al final todo vale especialmente cuando bildu les pisan los pies

son muchas las personas a las que sus medidas están condenando y a las que están dejando sin futuro sin opciones les niegan la voz les niegan el debate y les impiden

entender en cuanto a los criterios a los que se refería el señor rico yo no sé si se refería a los criterios científicos de jonan fernández

señora martínez usted tiene derecho a esa información que usted pide solicítela

cómo hay un procedimiento reglamentario que lo establece y proclama su derecho

le protege a usted y desde luego de paso a todos los grupos parlamentarios y preserva y así responde el gobierno a la obligación

eso es un buen momento es una buena forma política de actuar en relación con esta cuestión usted ha calificado nuestra

he tratado de buscar una salida a la falta de recorrido de su iniciativa porque

por esa reclamación parlamentaria en base al

de las informaciones parlamentarias en cualquier caso hubiese tenido el recorrido final esta iniciativa

apoyado si el gobierno no hubiese respondido a ese requerimiento

es trasladar una salida a esta situación y lo he hecho de una manera que yo he entendido

los técnicos acompañen a la consejera y fundamenten las decisiones que el labi toma o que el gobierno toma en relación con

que mejor pueda sustentar esas cuestiones en esas comparecencias yo creo que eso es lo que hemos visto y por eso me refería a los fallos del anterior consejo asesor pero era una salida y en cualquier caso señora martínez yo lamento mucho el

que algunos grupos dan en esta cámara con un cordón antidemocrático lamentable muchas gracias eskerrik asko barrio jauna

muy brevemente señora presidenta yo creo que le da igual intervengamos o que no intervengamos señora martínez yo creo que le da igual

los demás partidos les décimos y usted sigue con su perorata y usted sigue falta de transparencia le recuerdo semanalmente comparece la consejera en este parlamento no porque lo haya tenido usted

los dos partidos que sustentamos este gobierno le he dicho sabe lo que hubiera hecho el partido socialista

si usted no lo ha hecho es su problema otros grupos sí lo han hecho y van a tener esa documentación y la va a tener usted porque eso se traslada a la página web del parlamento vasco y es accesible para todos los ciudadanos no solamente para los parlamentarios y parlamentarias

pero hay una cosa que yo no le puedo consentir dice usted que estamos diciendo no a la democracia oiga señora martínez yo no sé

cuando en este país se luchaba de verdad por la democracia yo le puedo decir dónde estaba el partido socialista

lo mismo que hoy frente a quienes llegan a las instituciones con los motivos espurios

murriztea los datos de descenso de los usuarios durante la pandemia por lo menos los datos que hay

normal por una parte y lo explica por una parte el teletrabajo y también las semanas duras del confinamiento

ha bajado el uso del transporte público entre un treinta y ocho por ciento del tranvía de gasteiz hasta un sesenta y siete por ciento del tranvía de bilbao y entre medias tenemos pues la bajada por ejemplo

o de tuvisa de un cincuenta por ciento pero estos datos no pueden esconder otra realidad que es la masificación del transporte en determinadas horas punta y en líneas concretas hablamos por ejemplo del metro de bilbao especialmente en el tronco común

del propio tranvía de gasteiz de las líneas que van

al campus de leioa en la ehu tanto desde gasteiz como desde la propia ciudad de bilbao la línea de irún donostia del autobús el propio

durante el primer periodo de confinamiento medida por cierto que la síndica de la ciudad de vitoria gasteiz ya ha reiterado en más de una vez que hay que recuperar las frecuencias como están

otros medios de transporte o por ejemplo la línea bermeo bilbao también de bizkaibus y seguramente se darán en horas punta en otras líneas y en otros servicios que

aitortzen dugu eta ez dugu hori eskatzen antes de la llegada de la

y además esto es una cosa que oímos mucho pues había ya un déficit

el capítulo de ingresos y de gastos

en euskadi un déficit de en torno a doscientos setenta y nueve millónes de euros pero bueno también lo podríamos ver como una inversión y sabemos que el transporte

y más en estos tiempos de pandemia badakigu egoera aurrekontuen aldetik

orduekin vuelvo a decir que la medida que estamos reclamando es adaptar las frecuencias adaptar el servicio sobre todo en las horas de más

de un uso intensivo que generalmente suele coincidir con las

centros de estudio etcétera y además creo que el conjunto de medidas que

a esta iniciativa creo que eran perfectamente compatibles desde eh bildu además de la propuesta de frecuencias y de aforos se establecían otras medidas que de una forma quizás más sintética

con eh bildu son medidas que lejos de cualquier

hacer ver de una forma alarmista la falta de seguridad buscan reforzar la seguridad y sobre todo la sensación

miedo a mí personalmente me lo han llegado a decir y

aunque haya medidas de seguridad que las hay pero estamos proponiendo que se intensifiquen y también por supuesto la propuesta del grupo popular ciudadanos en cuanto a la información de la situación del aforo de estudiar

porque probablemente y de primeras no lo sería en todos los medios de transporte pero sí que

además la asociación internacional del transporte público habla de tres medidas fundamentales para minimizar minimizar perdón el riesgo de contagio en el transporte uno es el uso de las mascarillas que yo creo que es una medida que evidentemente aparte de ser obligatoria está generalizada pero

sensibilización en las campañas de su uso recomienda también la desinfección de las superficies de alto contacto

de araba sobre este mismo tema presentado también por nuestro grupo

araba el ejemplo de tuvisa es que las unidades se limpian una vez al día entonces nuestra pregunta

cuántas veces ni la frecuencia que se tenía que hacer si podemos mejorar este tema y si no se puede mejorar por qué no generalizamos una medida que en algunos medios de transporte está introducida y en otros no que es la colocación de máquinas de gel

junto a medidas que también en la transacción hablamos de ellas como la buena ventilación y la renovación frecuente del aire que en muchos medios de transporte se están haciendo pero cada día queda mucho por hacer en fin esto era la propuesta y seguramente alguien que desconozca por dónde venían los tiros con esta explicación seguramente

yo creo que también el martes por la mañana ofrecimos negociar una transacción al conjunto de los grupos políticos presentes en este debate

abiertos y abiertas a negociar los contenidos de esa transacción baina gobernua sostengatzen duten taldeen partetik bakarrik no podemos entrar jaso dugu erantzun bezala ni siquiera sentarnos a negociar a ver si en un tema que pensamos

ni siquiera somos capaces de sentarnos a negociar y la verdad que es un poco una mezcla entre pereza frustración y no sé si rodillo o que

creemos que constructiva creemos que nada alarmista creemos que totalmente

abierta para negociar que ha habido tiempo para hacerlo que por nuestra parte estábamos dispuestos a hacerlo que por parte también de otros grupos parlamentarios también se estaba dispuesto

o en esta materia o de qué pero no ha habido absolutamente ninguna voluntad de negociar por parte

en esta materia y vuelvo a decir estábamos dispuestos y de hecho

que estamos dispuestos de hecho la transacción que hemos firmado eh bildu y

recoge lo fundamental de las propuestas de los grupos enmendantes excepto las propuestas del grupo mixto y que sigue abierta también

gracias nosotros bueno queremos empezar diciendo que a día de hoy quien usa el transporte público

una necesidad de ir a trabajar de ir al médico

entonces claro situaciones como las que hemos visto en prensa en las que

con un montón de personas dentro sin poder mantener las distancias de seguridad sus medidas

contagiarse frente a este virus pues al final lo que hace es poner un poquito

sobre la forma de gestionar este tipo de transportes porque mire cuando en estos momentos cuando uno solo puede ir a trabajar y quizás no tenga la opción de tener el vehículo privado para ir a trabajar o no puede ir en bici porque está demasiado lejos pues no darle

o al médico o a estudiar en las condiciones sanitarias adecuadas pues al final

un agravio comparativo con otros ciudadanos y a mí me gustaría decir que en el transporte público tenemos que salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos y el derecho

también está si nosotros no les damos la oportunidades es decir las frecuencias adecuadas para que no haya no existan aglomeraciones incluso no o sea no puedan tener la distancia social suficiente para no contagiarse

es un servicio público en la enmienda o sea en la

nosotros en un principio lo único que vimos y presentamos una enmienda a la totalidad en la que añadíamos dos cosas uno que los

qué aforo tenía el vehículo o el transporte que iban a tomar para decidir

del transporte por vía férrea y tener una interlocución con el ministerio de transportes para que retomaran las frecuencias

por qué porque en estos momentos es importante que todo el transporte público esté en acción para dar soluciones a todos los que lo necesitan porque es importante que el transporte público

al cien por ciento incluso a ciento cincuenta por ciento porque ya sabemos que la situación económica no es adecuada en estos momentos

de dar servicios es lo que nos mueve dar servicios que garanticen el no contagio frente a este enemigo que es el virus hace un tiempo realizó una interpelación mi compañero

alavesas incluso habló de miranda habló

se veían incapacitados para poder acceder o para poder llegar a vitoria porque

el ferrocarril no solo el único transporte sino el que le ofrecía las necesidades que ellos

entonces claro importante y nosotros entendemos y acogemos bien la iniciativa de podemos

con bildu en la que hacen hincapié en las medidas sanitarias de seguridad de distanciamiento higiénicas

el aumento de frecuencias en el caso necesario mira yo ahora mismo me estoy acordando

es que no tienen más opciones deberíamos de dar opciones a personas que van a estudiar no van a ocio tienen que ir a estudiar

pero lo que no queremos es que enfermen por lo tanto es necesaria acoger las medidas que

de podemos y de bildu pues porque al final estamos para esto para dar soluciones y no generar problemas y cuando limitamos los aforos en el transporte público lo que tenemos que hacer es dar otra una opción

de hecho aquí nos movemos mucho con el tema del medio ambiente utilizar el transporte público es medioambientalmente sostenido sostenible perdón por lo tanto

del ferrocarril negociando con renfe todas las anteriores al catorce de marzo

para que los usuarios del transporte público

medidas de ventilación para que renovar el aire de todos los transportes públicos todas estas situaciones se tienen que hacer y las tenemos que hacer desde aquí las tenemos que negociar en las entidades

de españa con esto quiero decir que nosotros votaremos a favor de nuestra enmienda

la de podemos no recoge el transporte por vía férrea sin embargo

cuando menos curioso que en las afirmaciones que realiza el grupo proponente

propias de ellos por supuesto en relación al transporte público en esta crisis sanitaria sin mencionar estudio científico alguno sinceramente me ha dado la impresión que ha sido redactada como casi siempre disparando por elevación

y con el único ánimo de intentar situar a este gobierno en una tesitura de irresponsabilidad y concretamente al departamento de transportes públicos

tan irresponsable hubiera sido no tomar medida alguna como generar una alarma de forma absolutamente imprudente e innecesaria como es precisamente el caso de esta

traen ustedes a debate en la toma de decisiones generalmente suele resultar recomendable hacer un análisis de la situación

y de una manera proporcional y acorde a la situación concreta que se está viviendo es indudable que la pandemia ha obligado muchos servicios públicos y el transporte pues indudablemente no se ha escapado de ello este gobierno al igual contras instituciones y la totalidad de operadores que prestan servicio en nuestra comunidad autónoma ha hecho precisamente ese ejercicio previo de conjunción entre las medidas

había para ello para consensuar las medidas necesarias de adaptación del transporte público a dichas medidas y a la presente situación

el pasado cinco de noviembre miren señorías de podemos una vez más

adecuadamente el número de usuarios y las medidas que se han adoptado al respecto

para presentar esta iniciativa que hoy debatimos en esta cámara una vez más

de un gobierno del que desearían que hubiera realizado una absoluta dejación de funciones

una vez más no solo en los adalides de la responsabilidad sino mucho más allá de eso en los creadores de las medidas que van a salvar la humanidad y una vez más lamentablemente para ustedes vuelven a errar si hubieran analizado objetivamente los datos sabrían que se ha producido un drástico descenso una drástica reducción de los usuarios del transporte público lo que supone per se

de reducción respecto al mismo periodo del año anterior y a mayor abundamiento y respecto al descenso que se ha producido en el uso del transporte público

servicios en horas de mayor afluencia sabrán que este se sitúa aproximadamente en un descenso entre el veinte por ciento y el cuarenta por ciento por tanto

que se han adoptado desde la propia autoridad del transporte se han basado siempre en evidencias científicas sobre las conclusiones entre otras de estudios realizados a este respecto en distintos países como francia austria alemania o estados unidos

y entre las principales conclusiones que se han recogido en los estudios

la primera que el transporte público no es un foco de contagio

adoptadas el riesgo es del cero por ciento en viajes de setenta minutos pasando al uno por ciento en tiempos superiores de los más bajos de todos los clústeres estudiados casos que en ningún momento se repite o se dan en euskadi

de uso preceptivo marcado por el departamento de salud unido a las características del viaje no son de larga duración con carácter habitual los pasajeros hablan menos

una vez se instalan en el interior deriva en una gran limitación de la transmisión del virus desde las diferentes instituciones competentes así como por parte de los operadores

por carretera se han aumentado al máximo posible las frecuencias y puesto a disposición la totalidad del material rodante operativo se han instalado

de los convoyes se han ajustado las frecuencias en función del número de usuarios

en la totalidad de las estaciones no tranviarias se ha reforzado la seguridad en convoyes y estaciones para garantizar el cumplimiento obligatorio de las medidas establecidas se ha procedido al refuerzo de limpieza en estaciones y material rodante se ha reforzado el mantenimiento de los equipos de renovación de aire se han puesto en marcha instrumentos y campañas para la desincentivación del uso del billete físico se ha dado preferencia a los medios de pago diferentes al efectivo

en superficie y así mismo se ha procedido a tomar medidas adicionales como

la prohibición de ingesta alguna de comida y o bebida durante

o escalonamiento de jornadas en los entornos laborales que ayuden a aplanar la demanda en horas punta por tanto

que como en este caso lo único que provocan es una desincentivación en el uso del transporte público afortunadamente seguimos teniendo un transporte que cubre la demanda social y preserva de la mejor manera posible la conjunción entre la dotación de un servicio público esencial y que esta prestación se haga

para los usuarios y usuarias del mismo quizá hubiera sido mucho más constructivo hacer un llamamiento a cumplir con las medidas establecidas por los estamentos competentes

animar a la sociedad a seguir apostando por el uso del transporte público en detrimento del coche privado una vez más ustedes señorías de podemos han presentado

sin profundizar para terminar yéndose a los postulados de eh bildu que han recogido en su enmienda transaccional en su totalidad y su única aportación como grupo parlamentario ha sido incorporar el aforo del setenta por ciento llegan tarde porque lo que ustedes están solicitando ya se está haciendo y se hace de manera medida y proporcional en función

que estamos viviendo ya sabemos que como siempre para ustedes cualquier cosa que haga este gobierno será insuficiente porque para ustedes siempre existirá la posibilidad de aplicar aquello del y un huevo duro más pero en este caso

ikusi genezakeena elkarrekin podemos en la justificación de la proposición no de ley que debatimos hoy

afirma que el transporte público tanto urbano como interurbano sigue siendo un potencial foco de contagio

que no se sustentan por lo menos en su iniciativa en ningún dato y no solo eso sino que hay estudios que vienen a concluir justo lo contrario

en que la ciudadanía está optando por el uso del vehículo privado

en la seguridad del público pero tampoco aportan datos y además usted lo ha reconocido la utilización del vehículo privado también ha bajado como es normal yo bueno pues he preguntado y desde bidegi que es

vías de alta capacidad me daban unos datos del descenso de tránsito de los vehículos ligeros en las autopistas que ellos gestionan pues

en septiembre era menos un doce por ciento pero va aumentando en la medida en que la pandemia evoluciona hacia arriba o hacia abajo pues estos datos también cambian

los que empiezan a utilizar el vehículo son los que no quieren utilizar es que no podemos constatar quién es el utilitario de ese vehículo privado en ese momento yo creo que traer

sin basarse en datos pues pues es muy arriesgado señor martínez

pero bueno no le niego que haya personas que han optado por la utilización del vehículo privado cuando antes no lo hacían porque el miedo es libre y esas sensaciones que todos hemos podido

ciertas decisiones pero yo creo que aquí tenemos que ser un poquito más serios azaroaren bostean garraio agintaritzaren bilera bat izan zen

la campaña de que proponer mejoras en cualquier medida sea generar alarma proponer mejoras en el covid en el coronavirus lo hicimos en las primas con el lehendakari en el primer confinamiento lo hicimos en las reuniones con el lehendakari en el primer

desde que hemos entrado de nuevo en este parlamento y estamos en generación

en mitad de esta pandemia porque tenemos una responsabilidad y una altura de miras suficiente

pero no se lo permito que diga que elkarrekin podemos izquierda unida está haciendo

vuelvo a decir usted quiere tener una posición como la que tenemos usted y yo en el congreso de los diputados pero es que no encuentra porque elkarrekin podemos izquierda unida hacer propuestas y no estamos diciendo ni generando alarma ni hemos dicho

ni siquiera la iniciativa lo dice la palabra potencial es que no se manifiesta o no existe pero que tiene posibilidad de ser y he hablado de los informes que usted mismo ha hecho referencia

hablan también de una serie de semáforos diferentes en función de cómo vaya el transporte público

a escuchar de nuevo mi intervención en ningún momento que el gobierno vasco no haya hecho nada

en ningún momento hemos dicho hace falta hacer más cosas es lo único que hemos dicho lo mismo que hemos dicho en la hostelería vale respaldamos las medidas pero hay que hacer más cosas lo mismo que hemos dicho en otras cosas y además el tema de las frecuencias en hora punta lo dice

dos de noviembre recomendación número nueve en cuanto al uso del transporte público es recomendable

en las horas punta con ese fin es muy conveniente incrementar las frecuencias del transporte y el número de unidades en estas franjas horarias llame al señor lehendakari que estará presente en esta cámara que es el director único del labi y le llama
demagogo y alarmista eskerrik asko

adoptado por parte de los operadores y por parte de las diferentes instituciones implicadas han sido consensuadas dentro de la autoridad del transporte

también como por ejemplo en la de gipuzkoa en la que entre otros está el ayuntamiento de renteria que creo

a ver qué medidas adicionales a las que ustedes han propuesto aquí están tomando allí y yo les recomendaría que leyeran con atención la entrevista a mi compañera rafaela romero esta misma semana en el diario vasco de la que ha hecho mención

les pueda arrojar un poquito más de luz sobre esta cuestión señor fernandez de betoño me ha hecho mucha gracia cuando ha dicho usted en su primera intervención es que nosotros no queremos que se incremente el déficit del transporte público oiga pero en vez de fomentarlo han venido ustedes aquí a cavar la tumba del transporte público

el déficit sea mayor buena manera de contribuir a que ese déficit

por partes en base a qué determinan ustedes

son insuficientes díganme en base a qué díganme en base a qué yo le he puesto una serie de estudios encima de la mesa usted ha venido aquí diciendo que han venido a proponer mejoras y yo le pregunto pero qué mejoras

a debatir usted ahí ve algún tipo de mejora algún tipo de propuesta

las que los señores de eh bildu metieron en la enmienda que ustedes han transaccionado la han incorporado y que resulta que son las mismas recomendaciones que hacía el gobierno de españa

ustedes en su propuesta original han sido incapaces tan siquiera de meter esas mínimas propuestas de un gobierno al que ustedes pertenecen ustedes lo escaso que han trabajado esta cuestión por eso digo que muchas veces ustedes disparan por elevación

que no se trabajan las iniciativas que presentan y es que es una realidad

ustedes no esos señores ustedes qué propuestas han traído hoy a través

ni una ni una tan siquiera señor martínez zatón por favor una vez más se han vuelto a arrastrar por estos señores han asumido sus cuestiones y con eso además

las han hecho han sido los señores de eh bildu en fin me parece cuando menos bastante curioso vamos a dejarlo

de que no ha venido aquí a generar ningún alarmismo y que no me consiente bajo ningún concepto que yo diga

pues no solo se lo voy a repetir ustedes hoy aquí han venido a crear alarmismo han venido a poner

han venido a decir que el transporte público poco menos que es un problema y para colmo han terminado estigmatizándolo a través

han hecho hoy ustedes a la utilización y al fomento del transporte

ustedes hoy con esa actitud con esta pnl y con su segunda intervención

a incentivar el no uso del transporte público y hablaba usted de que despreciamos el debate mire nosotros no despreciamos el debate

ahora mismo yo no estaría aquí estaría sentado en mi escaño

hubiera hecho caso omiso a todas las cosas que ha dicho usted algunas de las cuales por ejemplo le podría decir que poco merecen el debate de esta cámara

acaso no es un desprecio por su parte no respetar que haya grupos parlamentarios que no quieran acordar con ustedes una propuesta de transacción porque no están de acuerdo con lo que proponen acaso es el espíritu democrático que le embarga

cuando ustedes nos están calificando como tal por el mero hecho de que nosotros no hayamos querido pactar

pueden venir aquí con las propuestas que quieran nos pueden decir incluso

en democracia pero por favor de una vez por todas que ya llevan unos cuantos años en política

eta bai esaten du que se han difundido mitos que sí han generado alarma pero que han sido unos mitos que también y

contestado rápidamente eta lehen datuak eman ditugu y que eso lo que hace es conseguir una estigmatización del transporte público eta hain

treinta y dos contra beraz erdibideko zuzenketa onartua geratu da

porque la sociedad exige a las instituciones que hagan de la violencia machista contra las mujeres una prioridad política es tiempo como nunca de disponer

y recursos de los servicios públicos y de las instituciones

en sus procesos de liberación recuperación empoderamiento y autonomía es imprescindible para que las mujeres recuperen el derecho fundamental a una vida que merezca la pena ser vivida con dignidad y seguridad

además para que nuestros pueblos y ciudades se fortalezcan como espacios de convivencia segura solidaria e igualitaria el parlamento vasco quiere solidarizarse con las mujeres y otras víctimas de la violencia machista asumimos nuestra responsabilidad en colaboración y coordinación con todas las instituciones

y de mujeres expertas y agentes de sociedad por todo ello el parlamento vasco se compromete a situar los derechos de las mujeres víctimas de violencia machista en el centro de todo el proceso de atención escuchando y atendiendo sus necesidades y demandas para diseñar

y garantía de no repetición behaketa hobetzea